trae a debate en esta cámara un asunto que nos parece de vital importancia

en las condiciones de vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas y que desde luego despierta un enorme interés

punto de vista una urgencia inexcusable por tanto en cuanto estamos teniendo ahora el debate sobre presupuestos y la asignación de los recursos públicos

así esta iniciativa habla del destino del recurso económico adicional por flexibilización del déficit acordada por el gobierno español y señalo el por

no carece de importancia durante mucho tiempo la prensa supongo que a través

en la trasmisión a los medios de comunicación se nos ha hablado de una negociación del gobierno vasco con el gobierno del estado español para aumentar el límite del déficit cuando en realidad lo que ha pasado ha sido una flexibilización acordada por

dado que la pretensión del gobierno vasco era elevarlo al uno coma tres y no dejarlo en el uno coma dos como finalmente ha quedado creo que hasta ahí no estoy diciendo nada que no sea cierto por tanto si alguien determina que ha existido negociación diremos que la negociación ha sido fallida por cuanto no ha conseguido su objetivo

un lo tomas o lo dejas porque en el fondo lo que ha habido es un consentimiento de bruselas o un permiso de bruselas para poder elevar

que en un ejercicio bastante lamentable de pérdida soberanía decidieron cedérsela

hace un par de años durante un agosto pero sí hablo de la capacidad democrática limitada o tutelada

no resultará extraño porque si algo hay en esta cámara son expertos en democracia lo acabamos de ver en el punto anterior se señalan con nitidez las diferencias entre lo que es demócrata y lo que no es demócrata aunque a uno que ha leído algo quizás no todo lo que le gustaría pero

determinadas definiciones de democracia le suenan o le llevan a la democracia orgánica que defendía el régimen franquista fascista era así como se definía así mismo orgánica más bien por sus órganos que por su capacidad de responder a las necesidades de su pueblo y de atender a las necesidades de su pueblo en cualquier caso este es un debate vivo y precisamente ahí es donde queremos centrar el sentido de la intervención porque en este debate

estamos hablando de la posibilidad de que estas instituciones se pongan en coherencia se pongan en la misma dirección y en el mismo sentido que cada vez más ciudadanos y ciudadanas nos reclaman no voy a decir yo si son mayorías silenciosas o minorías ruidosas pero que en cualquier caso cada vez más

que es señalar los límites con los que se encuentran señalar las dificultades o techos con los que tiene que acometer

y a partir de ahí decir que la democracia representativa la que se da cita en este parlamento es el único techo posible al que se puede llegar para luego abordar

reflexión si lo acordado en esta iniciativa es decir esos millónes

no se debería acaso contar con ellos no sería justo y positivo que además de encerrarnos en nuestra democracia representativa diéramos pasos hacia una democracia participativa hacia una mayor atención

vienen trasladando de manera intensa y decidida sé que alguien me dirá que en otras instituciones tampoco se ha hecho del todo no tengo ningún problema en señalar

una hoja de ruta o un trazado que nos pueda servir de aquí a años venideros por tanto no puede utilizarse como argumento defensivo esa

nuestra voluntad a trazar un camino que nos haga avanzar hacia mayores niveles de participación en la vida política y en la vida pública y en la gestión de lo público de los ciudadanos y ciudadanas ahí estamos dispuestos como eh bildu a dar cuantos pasos sean necesarios incluso a acompañar a quien no ha dado ninguno por muy tímidos que pueden parecer

otros en cualquier caso conocemos a través de los medios de comunicación el destino que se le va a dar a esos ciento ochenta millónes de euros un destino

diferenciada la que le corresponde al gobierno vasco y la que le corresponde a las diputaciones forales para no abrumar ni aburrir a nadie con datos porque además supongo que al menos los que llevamos este tema

que le despierta diría que de los ciento ochenta millónes cincuenta y seis son los que directamente

los que directamente ejecuta el gobierno vasco bien pues igual que sabemos

gobierno vasco pero hay una diferencia las diputaciones al menos una la de gipuzkoa para acometer ese plan de ejecución llevó ese debate a las juntas generales a su parlamento territorial y allí llegó a un acuerdo

para orientar o dirigir aquel gasto que le competía a él a ese ente a la diputación foral de gipuzkoa ejecutar nada de eso ha pasado aquí el gobierno vasco ha decidido con sus ciento veinticuatro millónes

entiendo y quiero pensar que de alguna manera coordinados o conectados con las

por eso le hablaba y hablaba al conjunto del carácter democrático necesario y por eso hablaba de la necesidad de profundizar en la democracia porque yo creo que habría sido bueno que pudiéramos

sobre cuáles son las líneas de actuación que entendemos más adecuadas para acometer aquellos objetivos que dice tener este acuerdo interinstitucional por lo menos en aquello

dicho sea de paso más amplia del conjunto de las partidas y por tanto con la que más se puede incidir de manera directa en acometer una apuesta por un determinado modelo

seguramente todos coincidimos en que los momentos que vivimos son difíciles y que requieren de situaciones de excepcionalidad o de emergencia otra cosa es que nos pongamos de acuerdo en cuáles son estas pero

nos señalaba no voy a decir que a modo de mantra porque no pretendo en ningún caso ser peyorativo con la expresión que utilizó pero que en cualquier caso reiteró

varios verbos hablaba de negociar pactar acordar consensuar

de su reflexión por qué no se ha trasladado esa voluntad por negociar pactar acordar consensuar a esta cámara con relación

porque si uno analiza el destino que se le está dando a ese dinero y no hablo ahora solo de del gobierno vasco sino también el de las diputaciones podrá ver con claridad

a euskal herria bildu se le tilda de generalista es más les molesta cuando nosotros décimos que algunas iniciativas que se tienen en esta cámara son buenistas cuando yo creo que el buenismo en sí mismo no es malo otra cosa es cuando se queda solo en eso también para aclarar y que nadie se sienta ofendido

pero en cualquier caso se nos acusa de generalistas de no tener una idea concreta o un modelo concreto de qué queremos para nuestro país y vemos por ejemplo como en este debate se dan las dos visiones una la que apuesta por macroproyectos por seguir ahondando en la matriz del modelo socioeconómico que nos ha situado en estos límites de riesgo para la dignidad social y personal

apuestas las propias para macroproyectos o hay otro proyecto que apuesta por lo local

que apuesta por las políticas públicas como cinturón que blinde la dignidad del conjunto de las personas y creo que gipuzkoa en sus proyectos ha sido otro ejemplo

es eh bildu luego explicaré por qué eso no es una lectura parcial no les daré el placer en esta

de determinar por qué lo hago si solo desde una óptica muy parcial o tengo algún dato objetivo que no es de eh bildu para decir lo que estoy diciendo que lo tengo y lo señalaré pero en cualquier caso yo no voy a poner en duda tampoco que ninguna de las formaciones políticas ni siquiera o tampoco la que ostenta la representatividad en el gobierno vasco no gobierne para las personas no me cabe ninguna duda no creo que esto sea el parlamento intergaláctico de mars attack seguramente gobernamos todos para las personas

y creo que con la apuesta por una determinada sostenimiento de matriz socioeconómico basado en las grandes infraestructuras y basado en la construcción

a empresas privadas para seguir construyendo obras a veces innecesarias

pues lo que estamos viendo es que se prioriza evidentemente a unas personas las que tienen la suerte algunos dirán que la capacidad y el mérito para nosotros la suerte y el privilegio en la parte alta de la sociedad de ser esas mismas clases altas de la sociedad que vienen soportando esta crisis parece que con mejor margen de aguante que la mayoría de la población que son los que están abajo y desde luego desde eh bildu intentamos pensar más

esa es nuestra voluntad ojalá se nos diga en esta tribuna que también la de todos porque entonces podremos ver cuál es la matriz que de verdad interesa más

mejor sus derechos y que garantiza mejor su desarrollo personal

y el sentido y la urgencia creo que está justificada por el momento político que estamos viviendo en la actualidad no solo por la grave situación que vivimos

el que determina cómo se tienen que gastar las partidas y hacia dónde se tiene que dirigir el gasto público cuando creemos que aquí tiene sentido esta iniciativa

y el sentido desde luego tiene que ver con aquello que también en este parlamento se repite de manera muy reiterativa por todas las formaciones políticas la necesidad de que haya un debate social de que haya un acuerdo de que haya una negociación que porque todos somos muy democráticos somos los más democráticos del mundo y yo precisamente señalando esa cuestión no voy a hablar de los estatutos de sortu que parece que son más leídos que las cincuenta sombras de grey voy hablar del acuerdo institucional entre el gobierno vasco y la diputación foral para el desarrollo de actuaciones de reactivación económica de proyectos de inversión

del documento que firmó el gobierno vasco con las tres diputaciones forales la de álava la de bizkaia y la de gipuzkoa en su punto segundo señalaba

que se debería al menos en parte dedicar esas cuantías de las que hoy estamos hablando a la reactivación economía y al empleo por eso he señalado antes

se atina más para la reactivación económica y el empleo insisto no desde criterios subjetivos

por criterios utilizados por otro pero en cualquier caso respecto al acuerdo

tenemos la sensación de que ninguna de estas iniciativas

y de transición desde la actual a uno nuevo se vayan a encontrar reflejadas esa es

poder debatir en este parlamento porque muchas veces

y muchas veces también se señala la debilidad argumental de uno u otro sin querer prestar atención a reflexiones más de fondo nosotros queríamos y queremos debatir sobre esto y queremos poder hacerlo en años venideros porque probablemente esa ampliación de límite de déficit más viendo la enmienda transaccional que han firmado con el partido socialista

sobre si se ha conseguido en una negociación o no

o en algo menos y en función de eso se disponen de más o menos recursos

que partiendo de lo local sitúa la reflexión en lo global el hacia dónde llevamos a este país hacia dónde queremos construir euskal herria si seguimos en la inacción

de continuar esperando a que broten no sé qué brotes verdes y nos permita poder hablar de incrementos de las tasas de desempleo o si por el contrario somos capaces de articular una defensa activa de nuestro tejido industrial algo que por cierto no hemos visto con fagor y nos da cierta pena y a partir de ahí construir una realidad desde luego mucho más justa y digna para los ciudadanos y también de la que se sientan partícipes por eso nuestra iniciativa tiene tres punto habla en el primer punto del destino

a que pueda ser debatido en futuras ocasiones a que se tenga en cuenta a los agentes económicos y sociales también a las entidades locales o a los entes locales a través de un progreso participativo porque

lo que redunda no daña y en cualquier caso porque creemos que se puede establecer como decía ahora mismo un protocolo para que esto no sirva de cara al futuro hacer de las cuentas ese instrumento de acción política pública

que pueda haber desde luego son mucho menos transparentes que la que permite la participación de los ciudadanos y ciudadanas besterik ez mila esker

breve efectivamente tal como se ha señalado eh bildu proponía básicamente tres cosas o quizás básicamente dos que son las reivindicaciones que están recogidas en sus primeros dos puntos por un lado proponía instar al gobierno vasco a que el uso del dinero adicional derivado de la flexibilización del déficit sea debatido

y por otro lado que se tenga en cuenta la opinión de los agentes económicos y sociales así como de las entidades locales a través de la puesta en marcha de un proceso participativo

al dinero adicional que vamos a tener como consecuencia de la flexibilización

no compartimos que no se pueda debatir en este parlamento el uso y el destino de ese dinero que proviene de la flexibilización del déficit por lo tanto en eso

estamos básicamente de acuerdo ya digo que nos hemos enterado a través de los medios de comunicación

de bilbao el parque tecnológico de zamudio también lo que va a hacer la diputación foral de gipuzkoa

etcétera a nosotros nos parece interesante y creo que es lo más importante de esta iniciativa que el destino el uso y el destino de ese dinero adicional

en este parlamento se pueda debatir en el resto de parlamentos también en los parlamentos forales creo que en aras a la transparencia y a la participación de los grupos políticos a nosotros nos parece absolutamente fundamental e indispensable aunque finalmente parece ser que esto no va a ser posible

en nuestra enmienda que este parlamento manifieste su voluntad que está para algo que está para debatir y que está para decidir qué es lo que se hace

lo que nosotros planteábamos en este primer punto manifestar

el gobierno vasco como consecuencia de la flexibilización del déficit sea debatido o decidido en este parlamento o en el resto de parlamentos

forales nosotros creemos en la democracia representativa pensamos que están aquí representados los ciudadanos vascos el conjunto de los ciudadanos vascos y por lo tanto no nos sumamos a esto de la participación de los agentes económicos y sociales

entiendo que aquí estamos representados y que nosotros representamos al conjunto de los ciudadanos

que este parlamento pueda debatir sobre ello y pueda decidir

aquello que nosotros consideramos que deberían ser las prioridades y señalamos el fortalecimiento del estado del bienestar fortalecimiento del sistema de protección social porque al fin y al cabo sigue creciendo en número de personas afectadas por la crisis el impulso de la actividad económica la creación de empleo estable digno y de calidad pero en todo caso más allá de las iniciativas concretas que pueda tener cada grupo político más allá de lo que cada grupo político

hacerse con este dinero adicional lo importante es que pudiera haber un debate y que nosotros fuéramos los que decidiéramos qué hacemos con este dinero

en nuestra enmienda de totalidad lo más importante en todo caso es que este parlamento pueda debatir y pueda decidir el uso y el destino de ese dinero adicional

presidenta señorías señor matute su intervención nos ha anunciado que algún aspecto fundamental o de fondo

luego yo también espero a que haga la segunda intervención para en mi segunda intervención

las cosas que opino por lo tanto en esta primera me voy a

a lo que es la esencia de su propuesta usted hace una propuesta en la que nos dice que ese gasto

de ese objetivo de déficit de esos recursos provenientes del objetivo de déficit déficit que se estimó en un principio y el que finalmente resultó sea debatido en el parlamento vasco y sea

contando con los agentes sociales con los agentes económicos y con las entidades locales bien a partir de esa esencia que usted plantea en esta iniciativa a mí hay algunas cosas que me llaman mucho la atención

y que en cierto modo no sé si son opiniones reproches o preguntas

pero en fin usted las considerará y en su turno de réplica espero que dé respuesta alguna de ellas

duda o la primera perplejidad que me asalta es que este es un acuerdo el que han hecho las diputaciones forales con

el ocho de mayo que se firma el treinta de septiembre y que su iniciativa se fecha el seis de octubre yo no entiendo nada yo no entiendo cómo un proceso que se abre un ocho de mayo no tiene tiempo en el mes de mayo junio julio agosto

para convertirlo en un debate público yo no entiendo cómo ustedes van y firman este acuerdo porque bildu ha firmado este acuerdo a través de la diputación

a través de la diputación foral de álava y lo han firmado conjuntamente yo no entiendo por qué ustedes no rechazan o posponen la firma de ese acuerdo

entre el conjunto de la sociedad para saber exactamente qué es lo queremos

sabiendo que alguna le va a caer dice oiga los argumentos que pueden darme en una actitud absolutamente defensiva

los argumentos válidos para usted y también los argumentos válidos para los demás

un proceso de participación en gipuzkoa y no es cierto que la diputación foral de gipuzkoa llevara este tema es más cierto o es únicamente cierto que fue

la que llevó a que se hiciera un debate en comisión de hacienda y por urgencia donde hay capacidad normativa plena para debatir estos asuntos porque la intención y la iniciativa de su gobierno en la diputación foral de gipuzkoa era como se hizo en álava

y efectivamente además contaban con el apoyo del partido nacionalista vasco porque ya habían suscrito un acuerdo y era coherente

no estamos de acuerdo con que se juegue a una cosa y a la contraria y encima se quiera dar

a hacer una firma sobre un documento en el que por qué hay que discutir solamente lo que afecta al parlamento vasco por qué no hay que discutir a las diputaciones forales o a los territorios históricos y no digo tanto lo que afecta desde el punto de vista

ese es un debate que también habría que hacerlo aquí pero ustedes no lo han propuesto en ningún momento

los dieciocho millónes de euros para gipuzkoa inmediatamente quisieron significar dónde había que gastarlos hubo luego una pequeña rectificación

ni debate con los agentes económicos ni debate con los agentes sociales ni debate con las entidades locales casi ni debate en las juntas generales esta es la realidad esto es lo que ha pasado por lo tanto las propuestas con una coherencia en el tiempo también hágala con una coherencia a la hora de tener

para poder discutir esto que desde el ocho de mayo hasta hoy no hayamos tenido tiempo de hacer este debate que usted haya esperado a la firma para ahora ponerse sobre los lomos de los demás para decirles oiga yo ya he decidido lo que yo quería y ahora quiero decidir lo que

cuando además cogemos la iniciativa es que ni se cuestiona el objetivo de déficit en su iniciativa no se cuestiona luego ha dicho alguna cosa aquí

o debatimos sobre el fundamento de su iniciativa que será lo que haya escrito y lo que nos ha propuesto

y usted no ha hecho ningún cuestionamiento en su iniciativa sobre el objetivo de déficit

ningún planteamiento ninguna crítica ninguna posición en relación a que siendo el país vasco una comunidad que ha cumplido con la estabilidad presupuestaria

ha sido profundamente maltratada por el gobierno de españa porque tenía derecho a tener un déficit mayor porque tiene una solvencia financiera mejor y mayor

para poder acceder a un gasto mayor y sin embargo tampoco en su iniciativa hay absolutamente nada de eso por eso nosotros hemos hecho una enmienda en la que a toro pasado señor maneiro también como explicación valga para usted

oiga es que alguien se retrae del convenio

diputado general de gipuzkoa dice que no vale la firma se rompe el acuerdo porque si se rompe el acuerdo estamos en el debate y si el acuerdo no se rompe no estamos en el debate

para no hacerlos este es el compromiso esta es la palabra

que hace un convenio y cuando hace el convenio dice ahora quiero discutir otras cosas claro esto no puede ser

efectivamente nosotros lo que planteamos es una orientación política y la orientación política que además está también en nuestro acuerdo suscrito con el partido nacionalista vasco y que lo discutimos en su día y que es donde se residencia la fiscalidad los servicios públicos

públicos puedan entrar en esta institución vamos a destinarlos prioritariamente a la reactivación económica y el empleo vamos a destinarlos prioritariamente

a las inversiones públicas eso ya está reflejado pero no nos venga usted aquí con un debate absolutamente tramposo en el que nos dice vamos a abrir el debate cuando tienen un convenio cerrado sellado y en ejecución

de presupuestos y es el momento de que discutamos sobre este tema

flexibilización por el gobierno de españa esaten duzu eta behin eta berriro

el gobierno de españa porque la pretensión de la negociación del gobierno vasco era del uno coma tres y por eso insisto en que es por el gobierno de españa y con el consentimiento

participación no se debería contar con los afectados y los recursos son para ellos eusko jaurlaritzak maiatzean

acordar consensuar pactar y negociar hortik

para qué personas gobiernan eso es lo importante

para qué personas gobiernan si solo gobiernan esaten izan dozu para aquellas que están en ciertas élites ba ez euzko alderdi jeltzaleak gobernatzen dau

a veces hasta cuando tiene usted en parte razón la pierde con la demagogia esa que hace yo pensaba que el debate hoy era si el parlamento vasco

sino que tiene que aprobar cuando el gobierno vasco tiene más ingresos y me da igual que sea porque puede emitir más deuda o porque tiene más ingresos de los previstos si es el parlamento vasco el que tiene que decidir dónde se gasta ese dinero y en este caso estaba pendiente de darle la bienvenida al club si es que llega a ser este el debate que he visto ya que no lo es porque yo recuerdo cuando este gobierno vasco ingresos mayores en un ejercicio de recaudación de más de cuatrocientos millónes de euros hace ya unos años de aquellos millónes de euros

y yo como en este debate llevamos solos muchos tiempo nos parecía hombre pues puede ser que por fin empecemos a debatir aquí si cuando el gobierno vasco tiene más ingresos de los previstos y me da igual el concepto se tiene que aprobar en esta cámara o no pero claro usted hace

que es que la hace inviable la hace inviable primero yo le digo

y pensamos y ya hace muchos años que lo venimos planteando

debatir y aprobar en qué se gasta el dinero que tiene el gobierno vasco

de un parlamento en cualquier país democrático decidir en qué se gasta el dinero pero claro lo que no puede venirnos es a echarnos el discurso de lo buenos que son ustedes lo demócratas que son lo transparentes que son

cuando se produce la reunión del gobierno vasco y las tres diputaciones

hay dos diputaciones que llevan los proyectos que dicen nosotros queremos esto y hay una tercera diputación que no lleva nada que es la suya la que gobiernan ustedes qué se somete a votación en las juntas de álava

se somete a votación dos cosas la ratificación del acuerdo firmado

cómo vamos a tener más ingresos tengo que elevar el presupuesto en la cuantía que me corresponde por la

eso hacen esas dos instituciones qué ocurre en la supertransparente que a ese acuerdo va sin presentar ningún proyecto la supertransparente es la que ustedes gobiernan llevan la proposición

por lectura única sin proyectos concretos es más con la mitad nueve millónes de euros para ayuntamientos

luego vamos a hablar de los dos modelos o de los tres modelos si usted quiere usted cree que eso es transparente

el pnv por supuesto sin hablar con nadie más ni con agentes económicos ni entidades locales ni nada de nada de todo lo que usted pide aquí que encima lo pide en unas fechas que si esto se hiciera así no sé si para el mes diciembre porque estamos ya en noviembre

es absolutamente inútil y por lo tanto lo hace inviable

con su segundo punto yo no sé si su democracia participativa pero que luego no participa nadie y se lleva por lectura única y con partidas generalistas de nueve millónes de euros para ayuntamientos

de gipuzkoa les dice a ustedes que no que de lectura única nada que se debate claro y luego hablamos de los modelos de si unos son para grandes obras y otros son para ayuntamientos y para qué ayuntamientos

y luego hablamos de

nos decía usted que unos usan

y otros no ha dicho micro dice locales mire le voy a decir en qué ha consistido el acuerdo que han hecho ustedes en gipuzkoa con el pnv lo han hecho los nueve millónes vamos a repartirlos en función de determinados ayuntamientos que nos interesan que casualmente no es donde vive la mayor parte de la población de gipuzkoa

por lo tanto cuanto usted hace la pregunta de para quién gobernamos

mayoría de los guipuzcoanos o no o solo para aquellos que viven en pueblines donde cada uno tiene su clientela particular y en eso sí son capaces de ponerse de acuerdo con el partido nacionalista vasco enseguida que es lo que hicieron en gipuzkoa eso sí sin hablar ni consultar absolutamente con nadie no sé si esa es su

forma de para quién se gobierna nosotros ya estamos comprobando para quién gobiernan ustedes

si usted piensa que se gobierna a favor de los trabajadores gobernando en contra de los empresarios porque

supongo que será usted capaz de explicarme quién va a crear empleo en gipuzkoa

esto queda muy bien de nosotros estamos a favor de los trabajadores y en contra de los empresarios queda fantástico queda muy bien

cómo y dónde van a trabajar o cómo y dónde van a encontrar trabajo porque yo estoy todavía esperando todavía esperando a ver su modelo y desde luego de democracias

exactamente cuando usted habla de democracia de qué democracia habla porque además nos conocemos hace años y

entiendo y además sé que es así que su democracia es la democracia popular que quedan en el mundo

ejemplos todavía que persisten del gran funcionamiento de cómo los derechos humanos se salvaguardan fantásticamente y además cómo los ciudadanos viven vamos son los mejores países del mundo para vivir lo que no entiendo

probablemente una de las razones por las que uno no va a vivir a esos países es porque cuando empiezan a molestarle lo suficiente los bombardean

tiene respeto por su propia vida o los bloquean de manera sucesiva y reiterada y supongo que también sabe de qué hablo pero por centrarnos ya en el tema yo no me atrevería con lo que ha hecho araba ustedes estén favoreciendo a pueblines

villabuena y samaniego conozco la zona conozco a las alcaldías

retórica reside la mayoría de la población de araba y por tanto tendrían

más cantidad por tanto no creo que el argumento sirva en cualquier caso sí le digo es

no favorecer a ayuntamientos que no estén gobernados por bildu en gipuzkoa dada la fortaleza de bildu en gipuzkoa y lo que sería realmente milagroso sería encontrar algún ayuntamiento gobernado por el partido popular en gipuzkoa

y el acto de fe pero supongo que no va a ser hoy en cualquier caso señalarle una cuestión

discutir de esa cuestión y no creo que eso sea un elemento perverso para nadie ni para ustedes ni para ustedes ni para nadie es decir yo creo que este parlamento tiene un sentido

que este parlamento es el lugar central y capital donde se tienen que discutir no sé que cosas o sí sé qué cosas que son fundamentales para la convivencia de este país

que no tiene que ver con esto que estamos hablando pero me parece razonable

no me parece demasiado honesto ya que ustedes hablan de la honestidad o usted apelaba a la honestidad y a la sinceridad y a no sé cuántas cosas y a las trampas

a acusarnos de una cierta dilación en los tiempos cuando ustedes no solo ustedes pero ustedes en la mesa decidieron que esta iniciativa no tuviera urgencia porque

estamos hablando de dinero y yo no es que vaya a esconder para esta segunda intervención no sé qué cosa mágica lo que yo he señalado es que lo que yo defiendo para sostener que hay dos modelos

en lo que otros dicen que determina qué crea más empleo y qué crea menos empleo y eso a lo que yo decía es la respuesta que el lehendakari da un parlamentario

sobre cuál es la cantidad de empleos que se van a crear con estos proyectos con los proyectos integrados en el acuerdo interinstitucional

y señala hay algunos por ejemplo otros proyectos de inversión como equipamientos sociales promoción de viviendas o fomento de la economía local son en cambio

dice también que son previsiones meramente orientativas pero que en cualquier caso atendiendo a los estudios

que situará entre siete coma uno y doce coma dos los empleos a tiempo completo durante un año por cada millón invertido la cifra parece escasa

son datos que yo no me invento que da el lehendakari y se los da un parlamentario que es usted

no yo y en cualquier caso cuando uno coge y lo aterriza luego en los proyectos por institución foral y cuando se habla y habla el lehendakari de los proyectos que dan más

la promoción de vivienda la inversión etcétera vemos que en gipuzkoa se habla del proyecto del fomento del empleo local con tres millónes ciento cincuenta mil del programa de impulso a las inversiones locales con seis millónes del apoyo a municipios con

la movilidad e infraestructuras viarias tres millónes trescientos mil equipamientos culturales y sociales tres millónes es decir aquello que parece que crea más empleo

de eso es de lo que hablaba con cómo destinamos el dinero y por qué a nosotros nos gustaría en este parlamento

este gobierno con ese montante que es el montante mayor destinado para invertir y cuando vemos que en el montante mayor el que tiene este gobierno lo que se hace es priorizar grandes obras

y no lo décimos por un afán de diferenciarnos nos encantaría que alguien dijera que podemos caminar hacia un modelo conjunto común de superación de esta realidad pero es que lo que vemos es una

porque se me acaba el tiempo con una cuestión yo nunca he dicho que ustedes no gobiernen para las personas y se lo he dejado bien claro lo que he dicho y sostengo es que sus políticas favorecen a determinado tipo de personas las que siempre han estado arriba

esto por llamarlo de alguna manera se ha convertido en un debate partidario bastante insoportable cuál es el meollo del asunto yo creo que

viene de responder a una pregunta que todos podríamos hacernos para qué queremos este parlamento para qué queremos

esa es la pregunta que deben hacerse especialmente los grupos que han firmado la transaccional que va a salir aprobada yo creo que ni siquiera es momento porque además no hay tiempo

el gobierno vasco con las diputaciones forales no es momento de debatir el contenido pero creo que sí es momento de reclamar que este parlamento pueda debatir y acordar

del déficit público y la pregunta por lo tanto es por qué no se puede debatir en este parlamento sobre ese asunto

en la que no recogen la posibilidad de que este parlamento debata y decida qué hacemos con ese dinero creo que esto es un principio absolutamente fundamental

incoherencias de eh bildu o de bildu o de la diputación foral de gipuzkoa que a veces me parece que no se distinguen bien unas cosas de las otras y más allá

esta iniciativa se haya planteado tarde y más allá puede ser o más allá de que esta iniciativa pues o que eh bildu no cumple en gipuzkoa

dice aquí o más allá de que firmara el acuerdo interinstitucional yo creo que nosotros somos grupos políticos parlamentarios y por lo tanto deberíamos tener la autonomía suficiente como para poder presentar en este parlamento una iniciativa para que se puedan debatir esos asuntos en fin la conclusión es que ustedes en su enmienda de transacción no recogen la posibilidad de que este parlamento

qué se hace con ese dinero público y yo creo que es lo más grave del asunto y yo sinceramente no entiendo la cuestión no entiendo por qué ustedes no incluyen esa posibilidad han acusado a eh bildu de incoherencia

han acusado de que la diputación foral de gipuzkoa no cumple lo que exige aquí el parlamentario de eh bildu

interinstitucional y creo que los grupos políticos tampoco han firmado ningún acuerdo interinstitucional yo creo que ese acuerdo está firmado por el gobierno vasco y las diputaciones forales y luego están los grupos políticos parlamentarios o junteros

a esta cámara por lo tanto en fin independientemente incluso de que se haya firmado ese acuerdo interinstitucional

la obligación nuestra de todos los grupos entiendo yo es exigir que se debata en cada una de las juntas generales y también en este parlamento qué hacemos qué uso y qué destino otorgamos a ese dinero público creo que es una cuestión esencial y puesto que ustedes acusan a eh bildu de incoherencia y de todo lo demás y puede que tengan ustedes razón nosotros creo que hemos presentado una enmienda de totalidad lo suficientemente clara si no les gusta la iniciativa de eh bildu voten a favor de la nuestra o incluso podríamos hacer un receso para poder llegar a un acuerdo porque creo que

la necesidad de que se debata en este parlamento sobre ese dinero nosotros estaríamos dispuestos pero lo fundamental yo creo que y el meollo del asunto es que

para debatir de cosas incluso que no son de nuestra competencia que sirva incluso para algo más que para perder el tiempo y pueda servir para decidir qué se hace

sí presidenta el reglamento de la cámara en lo que se refiere a plazos tiene

algunas iniciativas pueden perder frescura inmediatez la ventaja es que como hay plazos bastante largos a uno le permiten reestudiar lo que ha presentado y rectificar y hubiera sido una buena iniciativa por su parte haber retirado esto porque el problema

y voy a unir una contestación a usted con una contestación al señor maneiro porque el problema no es si se puede debatir en este parlamento qué gastos extraordinarios como decía el señor damborenea porque haya un mayor

a qué se tiene que emplear el dinero efectivamente eso es lo razonable que esta cámara debata sobre esa competencia

una propuesta del grupo bildu que lo que dice es que quiere que se abra proceso de reflexión de participación y de debate con los agentes económicos sociales entidades locales etcétera y además en este parlamento para ver en qué tenemos que destinar estos recursos claro yo lo primero que le exijo a bildu para que eso se pueda hacer es que denuncie el convenio

yo lo que no sé si el parlamento tiene que ser utilizado como una institución de persecución a acuerdos interinstitucionales

diputaciones forales y un gobierno que han llegado a un acuerdo y han llegado a un acuerdo conjuntamente

en qué se gasta y cómo se gasta todo entonces si se renuncia a ese convenio si se parte de cero si se dice oiga aquí hay esta cantidad de dinero

de cómo se reparte y a qué se reparte y a quién va dirigido el gasto

si el convenio va a funcionar ese convenio no puede podemos hacer aquí un debate hueco podemos hacer un debate para pasar el tiempo pero no podremos modificar si las partes no renuncian al convenio no podremos modificar ese convenio

primera exigencia a bildu que digan que no están de acuerdo con el convenio que digan que no están de acuerdo con cómo se reparte o que no están de acuerdo con cómo se gasta entonces se rompe ese acuerdo que lo rompan los que lo han firmado y cuando lo rompan los que lo han firmado alguna posibilidad y alguna virtualidad alguna eficacia

cuando ya eso está resuelto si por el contrario lo que se pretende es hablar hacia el futuro para los años siguientes cosa que no es el objetivo de su iniciativa por eso lo ha presentado de urgencia porque la quería y referida a esto aunque quedara preferente para años sucesivos pues puede ser otro debate

que los más autorizados o legitimados para proponerlo sean los que han suscrito un acuerdo y de qué manera

querían hacerlo por lectura única y sin ningún tipo de debate y fue ahí donde la iniciativa del grupo juntero socialista intervino para decir no no nosotros queremos hacer debate en cualquier caso tampoco se modificó mucho

y bildu y por lo tanto daban legitimidad a ese acuerdo y

alguna pequeña variación pero en lo fundamental lo mantuvieron porque ya estaba el acuerdo hecho y por lo tanto ya estaba resuelto entonces este es el planteamiento

de la capacidad de desdoblamiento de bildu pues que me parece muy bien oiga allí son junteros aquí son grupo

desdoblarse porque tendría que hablar los meses pares como gorka y los impares como maneiro porque usted es parlamentario grupo partido y todo a la vez pero en fin estos desdoblamientos cuando yo quiero soy ciudadano cuando quiero parlamentario

y han tenido en la diputación foral de gipuzkoa un comportamiento

o en lo que creo oportuno luego que no venga aquí a decir y ahora de lo que tiene que gastar los demás

es lo que tenemos que abrir sin embargo si usted considera

tendría que ser el debate porque usted no ha participado en el acuerdo

el recurso de haber presentado la iniciativa pero no ha presentado la iniciativa

porque la estrella del debate no es usted sino la equivocación de bildu

preposizioen joko horretan a para

muchas gracias señora presidenta yo voy a intentar

el primer punto dice que se insta al gobierno vasco a defender

nuestra comunidad tiene su sistema propio la comisión mixta y no tenemos por qué decirle al gobierno de españa qué déficit o no debe aplicar a otras comunidades autónomas sino negociarlo nosotros allí que es donde corresponde por lo tanto no estamos de acuerdo con el primer punto y el segundo punto

el dinero de más hay que aplicarlo a todo de todo de todo con lo cual pues muy bien pues estamos

para reactivación económica proyectos de inversión de investigación

no sé si se les ha olvidado algún departamento o alguna política que falte de incluir aquí y evidentemente esto es una broma vamos a ver

en el acuerdo interinstitucional no se habla de todo el dinero que va a salir de la nueva emisión de deuda se habla del dinero que el gobierno vasco acuerda con las diputaciones forales

directamente como quiera o no porque también hay otro acuerdo del que no se hablaba hasta ahora que no es interinstitucional pero es

que también especifica en ese anexo por lo menos en parte ese mayor déficit y esa mayor deuda a qué infraestructuras tiene que ir

que necesitaban elevar el techo de gastos y de ingresos de sus presupuestos porque este gobierno vasco

que realmente podía ejecutar y gastar este año por lo tanto doscientos hasta ochocientos millónes de euros más podía emitir sin necesidad de pasar por el parlamento porque el presupuesto prorrogado se lo permitía

durante este año es tener prorrogado un presupuesto con unos ingresos

con una autorización para emitir deuda que solo se la limitaba y cumplimiento de déficit que cuando se le eleva

ni siquiera ha necesitado venir a este parlamento a pedir permiso para emitir más deuda o para incrementar el presupuesto

este parlamento resulta que sí puede ejercer sus competencias y decide en qué se gasta el dinero que tenga además por cualquier concepto el gobierno vasco

discutimos el asunto de la morosidad y el grupo socialista trae esta iniciativa con la intención de solucionar un problema de supervivencia en euskadi del sector del transporte de áridos que no es menor afecta

de este sector son pymes que dependen del crédito a corto plazo para sobrevivir y necesitan por lo tanto cobrar en un plazo razonable la normativa les ampara

treinta días y sesenta compacto esto

en el de las obras públicas y no porque las administraciones no cumplan el gobierno vasco las diputaciones forales pagan en plazo en treinta días o menos los ayuntamientos no hay de todo pero el problema está dentro de la obra pública en la contratación

constructoras y sobre todo en la subcontratación hasta no hace

máximo de sesenta días pero como consecuencia de la crisis han decidido que esta era para ellas una buena forma de financiarse

a una empresa en treinta días en cualquier caso en menos de sesenta pero esa empresa no paga a

en doscientos días de ese orden es el caso de san mamés donde por ejemplo hay subcontratas que están pagando a doscientos y a trescientos días

sin necesidad de hablar de las empresas de referencia pero generalmente es en el ámbito de la construcción y

o una empresa pequeña de transportes esto es gravísimo porque

tienen que adelantar para funcionar estos empresarios el dinero del gasto cotidiano de los días que trabajan y eso supone hablando de promedios es un promedio estadístico oficial

al mes de gasto si tardan seis meses en cobrar estamos hablando de que ese transportista está adelantando

euros en ese semestre y además se cronifica porque si cobra un mes lo que trabaja ese mes

seis meses es decir tiene que adelantar un dinero que no tiene en una época de crisis

porque trabajan con márgenes cada vez más reducidos y

fácil el financiarse en las entidades bancarias por un lado porque no hay crédito fácil para estos casos por otro porque las empresas no le garantizan ante la

cuando consiguen algo de crédito porque los costes son inasumibles para los márgenes con los que trabajan eso significa lo que ha ocurrido que hace aproximadamente tres años había como

y no es una mera reestructuración del sector es que a veces se recurre a servicios de fuera de la comunidad a veces trabajar incluso más barato lo cual puede ser inexplicable el foco del problema está por lo tanto no en la ley la ley dice con claridad que son treinta días y el plazo máximo sesenta con pacto el problema está

a que los contratistas paguen en el plazo como

a los subcontratistas la forma de obligar a esto la hemos incorporado a la transacción en el primer punto que

al grupo nacionalistas vascos que es solicitar instar al gobierno de españa a que establezca un régimen sancionador porque

ha habido cambios legislativos se han introducido medidas en las administraciones públicas pero cuando alguien no paga y

no trabajas más si vas al juzgado y las cosas no están para perder muchos trabajos lo que ocurre es lo que está ocurriendo que

de inacción no por falta de trabajo sino por falta de cobro lo cual

entre otras cosas no porque sea injusto para estos autónomos estas empresas y para los trabajadores las tienen es porque es un problema para todos

si estos acaban desapareciendo prácticamente desapareciendo otros transportistas de cantabria de la rioja de valencia cubrirán algunos servicios

en la comunidad de procedencia y al final nada

en ese sector en riqueza en euskadi quedaría aquí por lo tanto la única forma de obligar es que se establezca por el estado que es quien tiene competencia un régimen sancionador de tal manera que cuando alguien no pague

sufra una sanción que le haga desistir a él y al resto de

las mismas empresas las mismas cumplen el plazo de los treinta días y aquí pagan a doscientos financiándose fuera del mercado financiero

así mismo en la transaccional pedimos instamos al gobierno vasco a que incorpore en las convocatorias de licitación o el pliego de condiciones como condición de ejecución del contrato

si no cumplen lo cual es muy razonable y viable también pedimos con carácter general que la administración por iniciativa propia y en contacto con el sector haga todo aquello

para luchar contra esta lacra de la mora en las subcontratas en las obras publicas y también por último que se estudie

cómo asegurar que el límite legal

de las que están marcadas legalmente porque cuantas más haya cuanto más fraccionamiento por más manos va a pasar el pago debido al último subcontratista que es el que trabaja y más va a tardar en cobrar y en condiciones más difíciles

esta transacción responde a la iniciativa del partido socialista de los cuatro o cinco puntos a todos menos uno y también a dos que eran comunes con la de nacionalistas vascos el que se ha eliminado que

que era que la posibilidad de transferir el estipendio del contratista al subcontratista en caso de mora en caso de que el contratista no pague que sea la propia administración la que legalmente

esto es verdad que con la actual ley del contrato del sector público pudiera tener alguna dificultad y entonces en la transacción

dejándolo como intención política porque creemos que vienen cambios en ese sentido en estos tiempos por lo tanto que el gobierno vasco y el gobierno de españa

porque no es un problema meramente sectorial no es un problema sino que en euskadi se está cargando a un sector comercial fundamental y sino lo pagaremos todos gracias

hay algún problema con el reparto de la transaccional que hemos firmado entre el grupo socialista y el grupo nacionalistas vascos

la transacción consiste en la proposición del grupo socialista al

el apartado bib pero bueno

el por qué de nuestra enmienda original

diecisiete de abril del dos mil trece tuvimos una comparecencia

y en la misma nos explicaron la grave situación que padecen tal como ha descrito el parlamentario vicente reyes los

su situación la gravedad de la misma y estamos convencidos que esta situación se

en otra serie de colectivos que trabajaban con los mismos contratistas las normas legales

y sabemos que las administraciones públicas cumplen su parte pero hay

contratistas que no hacen lo mismo con los subcontratistas y utilizan este retraso de pago para financiarse ya en

en febrero nuestro grupo trajo este mismo tema al parlamento y la iniciativa que en aquel momento impulsábamos nosotros pues obtuvo un amplio

y creemos que es de justicia lo que pedimos hoy y creemos que todas las administraciones

hacer que estas injusticias no se den sabemos que el gobierno vasco ya está trabajando en ello

que traemos hoy el primer punto instamos al gobierno de españa a establecer un régimen sancionador que penalice el incumplimiento de la legislación antimorosidad

estatal y a su vez en un segundo punto instamos a que el gobierno vasco y el resto de las administraciones

de nuevas cláusulas en los pliegos de contratación para que se garantice el pago

en tiempo y forma creo que es una transacción que no debería haber ningún problema para apoyarla por el resto de los grupos por lo que pido

de transacción firmada de hecho una iniciativa semejante presentó recientemente upyd

semejante a la que proponía el grupo socialista nos parece correcta

eskerrik asko maneiro jauna euskal talde popularraren ordezkaria barrio jauna zurea da hitza sí desde el escaño con su permiso señora presidenta

han explicado la transacción sobre la lucha contra la morosidad que mi grupo desde luego comparte anunciamos nuestro voto a favor de este tema también ya hemos hablado

en otras circunstancias y ahora anunciamos el voto a favor de la transacción muchas gracias

agradecer el apoyo a todos los grupos y al señor isasi

que obliga taxativamente al plazo máximo de seis años sin ninguna posibilidad de pacto de ampliación el que en el sector se siga haciendo es absolutamente ilegal pero lo hacen y no protestan

la única forma de luchar contra el incumplimiento de una ley es un régimen sancionador eficaz porque ya le decía que los dos estados que tenemos a ambos lados las mismas empresas

porque hay regímenes sancionadores que en este caso es competencia del gobierno de españa la única forma que tenemos para luchar

la sancionó un civilista quizá el mejor del siglo veinte en españa cuando dijo que el exceso de leyes

por su incumplimiento y la única forma de luchar contra el incumplimiento

muchas gracias señora presidenta señoras y señores parlamentarios yo también quiero ser breve en este último punto del orden del día

socialista y con el grupo nacionalistas vascos es clara

a lo que entendemos es una asignatura pendiente en esta cámara el proceso de integración europea se debe analizar se debe evaluar y eso

en cada ámbito institucional y político de la unión europea

importante hay que seguir profundizando en ese proceso imparable de unidad política europea y los actores se han generalizado el principio de subsidiariedad las políticas sectoriales

ante las instituciones europeas las posturas de los distintos gobiernos autonómicos en relación con políticas sectoriales con políticas territoriales

hacen que sea pertinente y que sea obligado veintisiete años después de la adhesión de españa a las anteriormente denominadas comunidades europeas

comunicación del gobierno vasco que lo fundamente que lo enmarque y que nos diga qué hace

qué se puede hacer en relación con nuestra presencia con el fortalecimiento de la unión europea la vida política la vida institucional y económica de euskadi han cambiado se han desarrollado han evolucionado

y sin ningún género de dudas beneficiándose de la pertenencia a tan importante ámbito de actuación perteneciendo a la unión europea

presentó una iniciativa similar a esta en dos mil once se aprobó la proposición no de ley se encargó al gobierno vasco

la confección de esa comunicación pero la disolución del parlamento vasco de manera anticipada impidió dos cosas impidió la presentación del documento e impidió la celebración de un debate procedente y asumido

por la mayoría de esta cámara veinticinco años después de esa adhesión

es un buen momento para volver sobre

dos mil catorce va a ser un año muy importante en la unión europea las elecciones europeas al parlamento europeo en mayo un renovado esperemos parlamento europeo

una posible convención europea

como pide y como exige algunos sectores entre ellos el movimiento europeo internacional y entre ellos también ámbitos como

del movimiento europeo pues están ahí como elementos de referencia y que pueden enmarcar también y que pueden justificar también nuestro debate nuestro balance nuestro análisis de situación

dónde estamos y por dónde vamos a caminar decía la justificación de aquella proposición no de ley que cuestiones específicas de nuestra propia realidad normativa se han visto influidas de una manera esencial por nuestra participación en ese marco económico y político

han sido muchos y muy importantes los vascos que han realizado sus funciones representativas en el parlamento europeo y en otros foros como el comité de las regiones el consejo de europa etcétera

en que nuestra delegación en bruselas ha ido realizando una labor de intermediación y adecuación de los intereses vascos a los que la unión europea representa

hemos sido informados periódicamente y finalmente también se señalaba que había más referencias de nuestro papel activo en el desarrollo industrial y político como por ejemplo es el que

perfectamente implicada con el parlamento vasco con el gobierno vasco con las diputaciones con nuestros principales ayuntamientos y que cumplió recientemente

a tener en cuenta para propiciar ese debate han sido muchas las opiniones desde la universidad

que impulsan a que debate sobre europa se celebren los foros políticos en busca de dar fortaleza

el parlamento vasco entendemos debe abordarlo debe afrontarlo con responsabilidad y desde luego esa era nuestra intención invitamos además al gobierno vasco

de referencia al gobierno vasco a que también haga esa reflexión la comparta en el consejo de gobierno pero bueno es una reflexión que el gobierno

a lo nuestro se ha producido efectivamente a lo largo de este año un cambio de gobierno

objetivo de una unión política perfeccionada y fortalecedora siga intacta

una proposición no de ley y la ha compartido en una transacción definitivamente con el grupo socialista y con el grupo nacionalista vasco y yo agradezco

ciertamente y sustancialmente el acuerdo que vamos a alcanzar

transacción dice que el parlamento vasco insta al gobierno vasco a que elabore y remita a la cámara para su debate en pleno o en comisión

ante la unión europea en el que se realice un análisis de situación y unas propuestas de actuación con especial referencia a lo desarrollado en dos mil trece en el marco de la materialización y el avance del proceso de integración europea

dato importante y una primera tarea que encargamos al gobierno y que nos encargamos también nosotros mismos

se insta al gobierno vasco a que a partir de dos mil catorce remita a la cámara al inicio de cada año para su debate en pleno o en comisión una comunicación anual con carácter anual sobre actividad sobre actuaciones

consagrar y oficializar esa información puntual y ese debate que podamos tener en esta cámara es un tema desde luego importante y que afrontamos desde la mayor responsabilidad como decía y como dice documento proyecto europa dos mil treinta retos y oportunidades y el informe al consejo europeo del grupo de reflexión sobre el futuro de la unión europea dos mil treinta

aunar fuerzas en torno a la unión a través de acuerdos entre las instituciones y los interlocutores económicos sociales

los locales los regionales en este caso aquí nos movemos que configuran nuestra realidad

con una sostenida capacidad de diálogo con la ciudadanía el apoyo de esta es básico en una situación de emergencia como la presente tanto por la dureza de la crisis y sus efectos en nuestra realidad social y económica como por los cambios estructurales que debemos realizar para

el futuro que deseamos por eso desde aquí desde euskadi desde su máxima institución del parlamento vasco bien podemos hacer este trabajo muchas gracias eskerrik asko

bai eskerrik asko el cinco de octubre de dos mil once se aprobó en este mismo parlamento la proposición por la que se pedía presentar una comunicación por parte del gobierno vasco

de análisis de situación y de propuestas de actuación sobre el papel que las instituciones vascas vienen desarrollando en la materialización del proyecto europeo más de dos años después el partido popular solicita dicha comunicación una vez más y exactamente en los mismos términos

iritziak eman ziren en dos años muchas cosas han cambiado en el ámbito europeo y también en las medidas que desde europa se han impuesto sobre el estado español y que han supuesto una intervención económica y política de facto

y sobre el gobierno vasco consecuencias que limitan aun más la capacidad de acción política y económica consecuencias que limitan aun más nuestro autogobierno y la manera de relacionarnos con europa hala ere

quiere desbloquear debates parlamentarios para traer o por lo menos intentarlo

de lo que suponen los últimos informes desarrollados en europa y cómo estos informes pueden afectar en su materialización al autogobierno vasco

debemos conocer cuál es la situación real en la que desde europa se deja al maltrecho autogobierno vasco debemos conocer las consecuencias de las decisiones que se toman en europa

se pretende en la iniciativa presentada por el partido popular fijar la mirada en el pasado y en la relación inversa al curso político

hacía europa sino todo lo contrario filosofia horri

eskatzen dugu ponentzia zehatza sortzea solicitamos que se constituya una ponencia que analice las consecuencias políticas fiscales sobre el endeudamiento y las consecuencias económicas que tendrá sobre el autogobierno y sobre el cupo la propuesta hacía una auténtica unión económica y monetaria

y que en octubre de dos mil doce el estado español aprobó

como ustedes ya conocerán tal informe se compone de cuatro pilares básicos el primero es sobre el marco financiero integrado el segundo sobre el marco presupuestario integrado el tercero sobre el marco de la política económica y el cuarto y último sobre la legitimidad democrática

estos cuatro puntos según el informe requiere de varios pasos previos que les den mayor legitimidad social entre los que se propone está la democratización de las instituciones

sin embargo hay una serie de puntos en esos pasos previos que deberíamos abordar en este parlamento y también se deberían de abordar por parte del gobierno vasco como por ejemplo el que se refiere

así se propone crear una conferencia parlamentaria para debatir

no tiene este parlamento intención de exigir participar en ese foro

qué consecuencias tiene esta medida otra línea de trabajo es la creación de redes de diputados nacionales que trabajen sobre una materia concreta lo que directamente deja fuera a este gobierno y a los intereses propios de este parlamento algo habrá que decir en relación a esto también

en relación al marco financiero ya estamos viendo en qué se concretan estas medidas lo hemos visto esta misma semana con kutxabank que ya ha abandonado sus dos objetivos principales el de ser

todo se cae en una semana por una directiva europea de esto debemos hablar en dicha ponencia que proponemos desde euskal herria bildu en relación al marco presupuestario integrado

y el tratado de estabilidad coordinación y gobernanza sino que se habla directamente de un avance cualitativo hacia una unión presupuestaria así se podrán establecer límites máximos para el saldo presupuestario anual y para el nivel de deuda pública

no se sabe bien en qué organismo pero sí se sabe bien que dicho organismo carecerá seguramente de un perfil democrático no es esto un tema que debe ser estudiado y trabajado en esta cámara teniendo en cuenta

qué clase de políticas creen ustedes que se van a implementar desde la europa depredadora de derechos sociales y vendida a los intereses financieros y encima cuando el único marco que se reconoce es el estatal el tercer pilar es el referido a la política

y como la realidad siempre supera a la ficción solo hay que ver la estrategia de las dos europas la enriquecida y la saqueada por los bancos la europa del norte y la del sur cómo creen que se ve desde alemania o francia euskal herria como un país del norte

tristemente ni nos ven ya que vivimos bajo la losa del estado español y del estado francés lo tristemente en lo económico las políticas que nos imponen son las que imponen a los países expoliados del sur

no deberíamos fortalecer nuestras estructuras como país para protegernos de esas medidas no deberíamos hablar sobre eso en una comisión que hable de la realidad europea

que no la tiene y que por supuesto tampoco la requiere para actuar impunemente europa impone

y sin embargo seguimos mirando hacia europa como la gran salvación pero pregúntenles ustedes a los portugueses griegos italianos qué opinan de las bondades de europa pregúntenle a la clase trabajadora de ese norte europeo qué piensa de las políticas austericidas

de estabilidad presupuestaria privatizaciones etcétera

pero lo más importante empecemos a preguntarnos aquí también sobre la legitimidad de las medidas que nos han impuesto preguntémonos sobre las consecuencias de todas esas políticas porque las nuevas medidas nos vienen ya y lo triste es que no se quiera abordar ese debate porque parecería que en el fondo de lo que se está hablando es

o no lo somos y no se puede replicar parece ser contra esta europa antisocial y mercantilizada sin que nos tachen

por ello hacemos debates sobre pájaros y flores y cuesta mucho entrar a debatir sobre las consecuencias de las políticas antidemocráticas que provienen de europa

seguro que el pnv comparte con nosotros y nosotras la preocupación y necesidad de dar respuesta como pueblo y poder hacer nuestro camino y por lo menos participar en pie de igualdad

para esto pretendemos crear la ponencia espero que ustedes por lo menos nos acompañen en su impulso eskerrik asko eskerrik asko lópez de munain jauna

miramos a europa como si a veces se tratara de una entelequia abstracta y malvada y la verdad es que los vascos participamos

europeísta desde mucho tiempo antes de entrar formalmente a formar parte de la unión europea eta

urtero porque al final el marco supranacional con más influencia sobre las políticas vascas es por su propia naturaleza la propia

y muchas veces nos preguntamos en esta cámara si realmente la europa que tenemos es la europa que queremos si la europa de la troika es la europa que responde a nuestra vocación

cuáles deberían de ser nuestras instituciones con qué competencias qué política debieran desarrollar y es verdad que con las políticas que se están marcando desde europa

con las instituciones europeas pero nosotros los socialistas estamos convencidos que la solución no es destruir la unión europea sino reformarla reforzarla en una palabra

entendemos que sería bueno fijar nuestras prioridades temáticas alineadas con las políticas vascas en el despliegue de las políticas de la unión europea así como nuestras prioridades globales que hacen referencia a las reformas estructurales

que también son las vascas nuestro destino indudablemente va unido al éxito de la unión europea debemos contribuir entre todos a superar la fuerte crisis que actualmente está sufriendo si queremos construir una europa de verdad tenemos que buscar un nuevo pacto para refundar sus instituciones democráticas de manera que sean verdaderamente representativas de la ciudadanía

de decisión suficiente como para plantear políticas comunes propias en economía en fiscalidad en lucha contra el fraude en defensa del estado de bienestar en impulso de planes conjuntos de empleo en fin en muchas y muchas materias en este sentido desde euskadi debemos propiciar una participación para incidir de manera eficaz en bruselas a través de diversos instrumentos como por ejemplo el comité de las regiones como por ejemplo también las formaciones del consejo abiertas a la participación de las comunidades autónomas y también incluidos los grupos de trabajo

los posicionamientos de la comunidad autónoma vasca se deben dirigir a las instituciones europeas como el parlamento europeo la comisión europea el banco europeo de inversiones

utilizar nuestra presencia en bruselas a través de la delegación de euskadi para la unión europea y de las redes europeas en las que los vascos las instituciones vascas

activa el debate que hagamos debe tener como objetivo primero marcar la posición de euskadi ante las determinantes políticas europeas que se están negociando en bruselas y que tendrán un impacto en la economía real en el largo plazo y posicionar a euskadi como un actor proactivo

un debate europeo en el seno del parlamento vasco y también en el conjunto de la sociedad vasca nuestro grupo se congratula de la enmienda transaccional que hemos alcanzado y que permitirá

barrio jauna zurea da hitza sí con su permiso desde el escaño señora presidenta

agradecer de nuevo a los grupos al señor uribe etxeberria la señora mendia y ahora también al señor maneiro el apoyo a esta enmienda de transacción efectivamente enmarcar iniciativa en un año importante dos mil catorce un año importante como todo el mundo conoce en relación con el proceso de integración de fortalecimiento de la unión europea queremos hacer con el debate que se suscite precisamente ese esfuerzo por fortalecer a la unión europea

unión política yo creo que lo oficializamos lo institucionalizamos el señor lópez de munain decía que fijábamos la mirada en el pasado

y el objeto de esta enmienda de transacción nosotros queremos debatir el año dos mil catorce y queremos hacerlo a partir del año dos mil catorce todos los años en función de los trabajos que las instituciones vascas vayan desarrollando yo creo que la posición de eh bildu la del señor lópez de munain se instala en ese análisis

de la galaxia que hace eh bildu todos los días bueno hoy le toca en este caso

actitud de antieuropeísmo que le caracteriza hacía una pregunta

supongo salvo cuando habla usted o cuando hablan ustedes

trabajando juntamente con el resto de la unión europea pero cuando les oyen a ustedes

se sorprenderán los alemanes y cualquier otro europeo se sorprenderá pero sabrá también

comunidad autónoma seria como esta que va a trabajar por el fortalecimiento de la unión europea usted se ha equivocado con esta iniciativa esta iniciativa pues desde luego es además una iniciativa su enmienda es una enmienda sesgada habla de una ponencia pero de una ponencia sesgada

usted que pasa que no entiende que haya habido beneficios no parece que no vuelvo a decir el discurso apocalíptico

hoy de bildu hoy le toca a europa muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

eskerrik asko contestar que simplemente eh bildu no es antieuropeísta no podemos serlo no podemos serlo

aunque preferiríamos otro tipo de europa significa menos españa y en ese concepto no podemos ser antieuropeístas todo lo contrario

de lo que va a suponer el informe realizado desde el consejo europeo tenemos lo que se ha puesto encima de la mesa son los cuatro pilares

la política europea y cuáles son las repercusiones que pueden tener para el hacer diario y para el desarrollo diario del autogobierno vasco no es para nada sesgado

en relación a esos cuatro pilares serán las que sean pero el no querer crear una ponencia para hablar de esos cuatro pilares

o por su parte es que no quieren abordar ese debate no tienen ninguna intención prefieren hablar cada año de lo bien que está haciendo

en relación a europa pero no quieren hablar en definitiva de las consecuencias para este gobierno y para este autogobierno de las decisiones que se toman en europa

de política económica de política financiera fiscal presupuestaria y de todos los temas le decía al señor uribe etxebarria le quería presentar una pregunta

europea en relación al informe que he traído aquí las preguntas eran dos la primera era

y presupuestaria como la comunidad autónoma vasca y la comunidad foral de navarra y cómo se engarzarían en el sistema que se prevé diseñar

que poseen capacidades y competencias propias en política fiscal

a la hora de establecer mecanismos de toma de decisiones y la respuesta que se dio y que viene siendo la de siempre y que creo que es la que deberíamos de empezar a meternos en la cabeza

desde las instituciones proeuropeístas que tiene este gobierno o pertenecen al gobierno la respuesta fue la siguiente

no interviene en la distribución interna de competencias en el seno de los estados miembros de la unión europea

eso estamos hablando que esos señores que gobiernan en madrid son los mismos que están reduciendo las competencias y están asumiendo para sí mismas las pocas competencias que se pueden ejercer desde este parlamento y desde este gobierno

sobre todo si queremos pertenecer a esa europa o si nos vemos algún día como entes

de esa europa tendremos que empezar a poner los mecanismos que nos puedan hacer

y no son otros que sobre todo empezar a observar y reclamar la participación el estar y sobre todo exigir que no sea el gobierno español los que tomen en consideración los temas vascos

lo que se pretendía traer aquí cuáles son las consecuencias directas de ese informe y de ese tipo de políticas para el autogobierno vasco

de esos ejes fundamentales de cambio que se traen para europa besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko zuri lópez de munain jauna

imaginara bien que el informe que alude no es la carta fundacional de la unión europea con esto quiero decir que los temas que usted está planteando aquí evidentemente nosotros lo hemos tratado y los venimos tratando desde hace décadas desde hace muchas décadas

en este mismo parlamento sobre la convención europea por cierto

votó en contra de la propuesta que el partido nacionalista vasco junto con alternativa y eusko alkartasuna presentó en esta cámara

con esta ponencia que usted propone ni tampoco con el informe al que usted alude

tendremos oportunidad sin lugar a dudas de hablar de todos esos temas en profundidad y de una manera extensa en los próximos meses porque es un debate

que mantengamos unos y otros tendremos buenos espacios yo creo que de acuerdo en todo caso yo creo que

lo que vamos a aprobar hoy lo más importante en mi opinión es que el parlamento vasco institucionaliza un debate monográfico sobre la unión europea sobre la base de un informe que remitirá anualmente el gobierno vasco donde describirá todas las actuaciones que ha desarrollado gobierno vasco

en la medida de lo posible en relación a la unión europea y ahí tiene cabida todos los temas que usted plantea porque evidentemente nosotros los vamos a plantear también eskerrik asko